resúmenes de las intervenciones que han tenido lugar en la primera sesión

hay una petición al gobierno de más actuaciones aunque creo que con diferentes visiones hay un respeto por la apuesta por el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y las políticas sociales el empleo es la gran demanda social y también del parlamento aunque los puntos de vista son divergentes he escuchado

el calificativo de autocomplaciente en ningún caso he dicho que no hablaremos de salida de la crisis hasta recuperar el empleo perdido en tiempo de la crisis

y hay una coincidencia en la exigencia clara a eta para el desarme definitivo que respaldo y trato de promover con una propuesta de fin ordenado no de eta sino de la violencia y del terrorismo

un compromiso social por la convivencia apunto que se ha criticado la actitud del gobierno en materia de víctimas del terrorismo y se hace a mi juicio retorciendo los argumentos y haciendo una lectura de la posición del gobierno que para nada se ajusta al espíritu de nuestra actuación pero daré cuenta de ello también en cuanto al tercer eje reitero que la ponencia de autogobierno y los partidos políticos están demostrando que todavía no hay una posición común de consenso de cara al futuro político de euskadi y esa falta de proyecto común se ha reflejado esta tarde en las intervenciones

el reconocimiento del incumplimiento de esa propia legalidad también propuestas de unilateralidad para avanzar en el proyecto político de euskadi

en sede parlamentaria las bases para un nuevo pacto político de futuro hasta aquí

sin entrar a detalle de lo que cada uno de los portavoces ha dicho pero sí deteniéndome en algunas de las cosas principales que a mí me resultan de sus intervenciones he apuntado no obstante creo que la mayoría de las cuestiones que los diversos portavoces han dicho así

ha empezado por hacer un análisis de los resultados dos mil doce dos mil quince diciendo que iba a hacer un balance serio y riguroso y ha calificado al gobierno de un gobierno inerte insensible incapaz inactivo ha profundizado en

la pobreza ha criticado que no hemos implementado ninguna medida reformadora ha entrado en el capítulo también

del conflicto vasco como que nosotros fomentamos el conflicto vasco la tesis del conflicto vasco

ha planteado también la deuda de la administración y nos ha acusado al gobierno vasco de echar las culpas al resto y permanentemente echar las culpas al resto en el eje de paz y convivencia

ha tachado también con un concepto a mi modo de ver no voy a enjuiciarlo

campamento de verano la relación entre víctimas y presos ha manifestado también su disconformidad con la reunión con los alcaldes y la crítica por haber dejado fuera de esa reunión al partido popular cuando usted sabe bien señor maneiro como todos los portavoces coordinadores

y fuera de esta cámara que yo he dirigido un escrito a cada uno de ustedes

con los alcaldes donde hubieran sido o hubieran tenido lugar víctimas mortales y resulta que no hay alcaldes en municipios alcaldes del partido popular en municipios donde haya habido víctimas

señor maneiro para que nosotros contemos con el partido popular y para que cada alcalde o alcaldesa del municipio donde hayan surgido o

mortales y haya representación del partido popular en aras a ese consenso se trabaje también obviamente con el partido popular nos ha

animado a romper relaciones entiendo que a romper relaciones con el grupo parlamentario eh bildu

por no coincidir tampoco en las propuestas firmadas con eh bildu

en todo caso ha pasado usted al capítulo del autogobierno y también ha entrado usted con otro concepto que es llevamos veintitrés años

que reivindicamos derechos que no existen que yo soy el representante ordinario del estado y que sin embargo estoy agazapado con

política para seguir viviendo del cuento ha entrado también en el ámbito del cumplimiento del estatuto en su versión nacionalista

ha hecho referencia a la seguridad social y a la cobardía política de este gobierno y de este lehendakari por no haber presentado una propuesta concreta sobre el nuevo estatus y ha terminado por decir que

estas son las cosas que usted ha dicho señor maneiro señor maneiro yo no comparto en absoluto su visión catastrofista de la situación actual vasca a mí me da la impresión cada vez que yo intervengo en tribuna y le tengo que responder a usted que

para repetir cuántas veces sea necesario en esta tribuna porque usted en esta tribuna y no digo que los demás no nos repitamos

cada intervención repite la misma cuestión por lo menos cuatro veces y me da la impresión a mí de que usted escribe lo mismo que ya tiene escrito para en su intervención insistir hasta cuatro o cinco veces

en todo caso usted me pide datos y le voy a dar datos objetivos en diciembre del año dos mil doce

en diciembre del año dos mil doce en agosto de dos mil quince hay ciento cincuenta y cinco mil setecientos personas sin empleo

titulares acusando al gobierno de inactividad de incapacidad de insensibilidad quiere usted titulares pues le voy a dar titulares titulares que son constatables euskadi es líder en educación euskadi es líder en renta disponible por persona

en sanidad euskadi es líder en protección social y todo esto ante lo que es su visión catastrofista de la situación actual vasca y no lo digo yo lo dicen informes objetivos euskadi tiene la menor tasa de paro

ese es un discurso ya viejo señor maneiro ese sí que es viejo

que no se corresponde con la realidad por mucho que lo repita no se va a convertir en verdad ha dicho usted que este lehendakari es prescindible bueno pues quién es prescindible o no

lo deciden las y los vascos con su voto poniéndonos a cada cual en nuestro sitio y decidiendo quién es relevante y creo que hasta el momento hay una diferencia sustancial en el apoyo que recibe el partido nacionalista vasco y todos sus candidatos y candidatas

upyd señora quiroga ha empezado su intervención por hacer un balance de tres años

y me ha acusado a mí de no hacer ese balance de tres años estamos en el debate de política general en el año dos mil quince

usted ha empezado por decir que yo dije en el año dos mil doce que era el reinicio de euskadi y se ha referido nuevamente a los datos de paro a los datos de producto interior bruto se ha referido también a las competencias propias del gobierno vasco a las competencias contempladas en el estatuto

he entendido y si lo he entendido mal y me he equivocado pido disculpas

no queremos desarrollar las competencias propias contempladas en el estatuto se ha referido a la actividad legislativa y ha hecho mención simplemente a las cinco leyes aprobadas de las que el gobierno vasco ha aprobado y ha presentado al parlamento vasco

pero también le tengo que decir está bien referirse a las aprobadas

pero incluso le diré que entre las aprobadas entre las cinco aprobadas en ese bagaje escaso de producción legislativa que usted ha denunciado hay tres que ustedes han recurrido

ejecución presupuestaria freno de mano echado en el gasto

ante el pinchazo de la recaudación nosotros hicimos malas previsiones o no hicimos las inversiones para cuadrar el gasto o no estamos haciendo las inversiones para cuadrar el gasto las previsiones para el presupuesto de este año dos mil quince se aprobaron en el consejo vasco de finanzas

y se aprobaron por unanimidad como siempre se han aprobado y en el consejo vasco de finanzas había un representante del partido popular el diputado general de araba en aquel momento en aquella legislatura municipal foral por lo tanto no sé si los acuerdos adoptados por unanimidad es decir por todas y todos o por todos en aquel caso presentes en la reunión del consejo vasco de finanzas como previsión no sé quién acertó y quién se equivocó pero en todo caso somos concientes de lo que son los datos de la recaudación hasta el mes de agosto

sean mejores a finales de este año ha hecho usted mención al techo de deuda y ha hecho una apelación en varias ocasiones a la bajada de impuestos se ha preguntado por el diálogo social y para cuándo un acuerdo y ha

sindicato que bloquea pero que no podemos estar parados y ha hecho también una acusación en cuanto a que

el planteamiento de adegi y que esta es una responsabilidad de gobierno

ha hecho una mención también a cinco años mirándose hacia dentro sin hacer referencia obviamente que de esos cinco años los dos primeros por lo menos

socios parlamentarios de un gobierno con mayoría absoluta del partido socialista con el partido popular se ha referido también a datos con respecto a los jóvenes

pasar de la confrontación a la colaboración la pérdida de fondos europeos en la formación profesional básica el euskera y lo ha calificado usted

el consenso entre nacionalistas aquí no hay consejos vascos plurales

que acuerdan también cuáles son las estrategias compartidas siendo que los miembros de esos consejos pueden ser nacionalistas como pueden ser no nacionalistas vascos

ha planteado usted no esfuerzos por igual y se ha preguntado por el fin ordenado de eta no yo le he dicho

ordenado de la violencia del terrorismo lo que estamos planteando que es diferente

en el capítulo de nuevo estatus prolongar la agenda de reivindicaciones para prolongar nuestra vida política

es decir que nosotros vivimos políticamente solamente en base a lo que es nuestra reivindicación política sí así es como nos premian

solamente por esa cuestión en todos los territorios incluso en los territorios que ha gobernado el partido popular nación foral y usted con una escenificación como me acusa a mí también de las imposturas o de las posturas que tengo aquí en tribuna

ha calificado usted como rancio viejo luego entraré también en esa cuestión y ha demandado el abandono de la queja de la recentralización y nos ha acusado de inacción y de parsimonia bien

y le reitero que dijimos que en los años dos mil trece dos mil catorce

y que la recuperación económica se iniciaría en dos mil quince y así está siendo me pregunta usted si estoy satisfecho con las medidas económicas y sociales que hemos adoptado y le tengo que decir que sí estoy satisfecho con las políticas sociales que hemos puesto en marcha y que nos han permitido contener y mantener niveles de cohesión y equilibrio social muy por encima de nuestro entorno

que ya lo he dicho aquí en reiteradas ocasiones el cuarenta por ciento de todo el dinero que en el estado se destina a renta de garantía social se da aquí

supongo que no lo dirá enserio en dos mil doce usted ha dicho esto sí usted ha dicho esto el producto interior bruto descendió en uno coma seis por ciento

en dos mil doce sí señora llanos lo ha dicho corrija en su segunda intervención si quiere yo respondo a lo que usted ha dicho

descendió casi el seis por ciento y en el año dos mil quince esperamos un crecimiento superior al tres coma cinco por ciento en el año dos mil doce había ciento sesenta y nueve mil personas inscritas en lanbide como demandantes hoy hay

se ha referido a los datos de ejecución presupuestaria y también en los datos provisionales hasta el verano como he dicho y a fecha de hoy

le voy a dar el dato general a fecha de hoy el gasto comprometido en inversión es

a fecha de hoy del setenta y uno por ciento en dos mil catorce el gasto comprometido fue el noventa y siete coma dos por ciento en todo el año y a fecha de hoy veinticuatro de septiembre estamos en el setenta y uno por ciento sobre los datos de paro registrado ya he hecho referencia antes ha hecho usted mención también al diálogo social

creo que en alguna ocasión también me he referido a las cuestiones que tienen que ver con el diálogo social y en concreto a que escasos meses después de que yo fuera lehendakari

bilaterales que se habían venido celebrando yo convoqué una reunión con la representación nacional de las organizaciones patronales y también con los sindicatos para abordar el tema de la ultraactividad sabe usted cuál fue el resultado que no el de esa reunión sino el de

no la nacional sino las territoriales no secundaron lo que había sido un preacuerdo en relación a lo que era ese tema en cuestión y yo lideré

este gobierno ha seguido en conversaciones y en reuniones bilaterales para promover el diálogo social o quizás sería mejor decir el diálogo tripartito instituciones gobierno administraciones y sindicatos agentes sociales y en concreto además de las acusaciones que se vienen haciendo de manera injusta por parte de los sindicatos de la ertzaintza y ahí hemos dicho también en cuántas reuniones

en trece reuniones cuando menos de la mesa ciento tres

podríamos decir por ejemplo que en nueve meses ha habido reuniones cuatro reuniones de mesa sectorial que en empleo por ejemplo y en relación ya a la mesa de diálogo tripartito o mesa de diálogo social

dos reuniones una en julio otra en septiembre y está prevista otra para el mes de octubre y hacemos determinadas cosas con discreción señora quiroga para buscar el efecto oportuno

posible que es el que nosotros trabajamos señora mendia ha empezado usted por hacer un recordatorio de que queda un año

que los otros dos más o menos pero que no pierda otro año

lo que puedan ser medidas que supongan recortes y plantean como socialistas las alternativas a los recortes e insiste en que no a acuerdos

criticado usted que hemos renunciado yo he renunciado a negociar la tasa de reposición creo que lo debería saber usted no es cierto

en cuanto a reuniones que yo mantuve con el presidente del gobierno español rajoy

una de las principales fue el de la tasa de reposición que en un momento estaba en el cinco por ciento y se incrementó al diez por ciento cuando yo reivindicaba que se incrementara al cincuenta por ciento

no será porque yo tampoco no reivindiqué el incremento de la tasa de reposición ha hecho referencia al ces y sobre el ces podríamos hablar

sobre los informes del ces que han motivado también encuentros del gobierno vasco con el propio consejo económico y social para saber

y cómo se trasladan a la opinión pública esos informes del ces si son con consenso

o son informes sectoriales que el ces los da como válidos

y permanentemente hace referencia a la senda dejada por el partido socialista de euskadi

en todo caso señora mendia la senda que dejó el partido socialista de euskadi no contó con un apoyo suficiente de los vascos y vascas para que el partido socialista de euskadi como fue con ausencia de la representación de la izquierda abertzale en la legislatura pasada como gobernara con el apoyo del partido popular

con una referencia a las no fotos y una memoria y convivencia sobre bases sólidas sobre principios firmes en una reivindicación también de la discreción y que está de acuerdo con lo que décimos pero en nada con lo que hacemos

desgraciadamente desde que no ya en relación al plan de paz y conviden del gobierno vasco

de la ponencia de paz y convivencia aun cuando la ponencia de paz y convivencia con el compromiso de la representación de eh bildu quisiera comenzar con el mismo suelo ético que se aprobó en la legislatura pasada bueno ha planteado la revisión fiscal consensuada

la actualización del estatuto desde la legalidad reformar el estatuto para reforzar los derechos y ha terminado por decir que efectivamente hay mucha tarea

a un gobierno paralizado y que no tenemos respuesta a los desafíos que tiene este país

cada cosa a su manera pero me quedo con que usted ha dicho que euskadi es más rica pero los vascos más pobres y yo reconozco

después de siete años de crisis así lo he dicho también en mi intervención de esta mañana

cuatro de los cuales estuvieron ustedes en el gobierno casi por cierto y he dicho en el discurso de esta mañana también que no podremos dar por finalizada la crisis hasta que no recuperemos la totalidad del empleo perdido estamos de acuerdo pero también hay que contar la otra cara de la moneda y contar la otra de moneda supondría poder decir también que el gasto medio por persona en dos mil catorce era

dos mil quinientos cincuenta y tres más que la media del estado y escuchando

a veces puede dar la sensación de que el mundo empieza y acaba con el partido socialista de euskadi yo le reconozco su contribución y sabe que le agradezco se lo agradezco y lo hago cuantas veces tengo ocasión de decirlo públicamente incluso en este mismo foro

no presenta un plan novedoso para el empleo nos dice

de planes de formación a personas en paro y señora mendia son planes todos ellos que están en marcha y tenemos aquí el desglose de lo que es el programa marco por el empleo y la reactivación económica

dos mil catorce y dos mil quince lo que tenemos previsto y lo que estamos ejecutando y las previsiones de impacto que teníamos para el año dos mil catorce y que las que tenemos para este año dos mil quince y que se vienen cumpliendo

dotarnos de un fondo de cohesión social y le puedo adelantar que este fondo está comprometido en el consejo vasco de finanzas con diez millónes para el

y evidentemente todas estas medidas son mejorables estoy de acuerdo ha terminado por decir que quiere un estatuto más fuerte y más seguro bien pues trabajemos trabajemos

gaztelerak ley de empoderamiento de la ciudadanía

aipamenaz batera ley de empoderamiento de la ciudadanía zenbat eztabaida izan ditugu legebiltzar honetan

aipamena egin baitut y veo que esta cámara también se pone a la cabeza en buscar una solución a este problema

de que sus hijas vivirán en un escenario de paz

que estamos en el escenario más cercano de toda nuestra historia para alcanzar la paz y estoy de acuerdo

estoy de acuerdo y le digo que comenzar el camino es fácil comenzar el camino es fácil pese a que también se dice que comenzar el camino es lo más difícil

y la decisión no está en manos de los demás sino de eta de la misma manera que eta declaró unilateralmente

de la acción violenta ahora esta tarde o mañana

la posibilidad de anunciar unilateralmente el desarme y la disolución y esa es la vía más rápida para acabar con el ciclo de la violencia

nuestros hijos e hijas y nietas y nietos de algunos o algunas de quienes están aquí también de muchos de los aquí presentes vivan en un escenario de paz hiru arlotan aurkeztuko dut

yo no soy eufórico con nada y menos con la evolución de la economía con nada con nada
la evolución es positiva pero hay muchas incertidumbres isiltasuna mesedez

no se pueden negar los aspectos positivos de la situación actual estamos mejor que hace un año y medio y mejor que hace dos pero tenemos un largo camino por delante para recuperar el empleo perdido lo he dicho

he reconocido nuestra preocupación por la inestabilidad e incertidumbre percibida a raíz de la crisis china incluso con los mensajes de ralentización en los países emergentes

he querido hacer hincapié en que nuestra preocupación está en las dificultades de las personas y familias que no tienen empleo o que cuentan con un empleo precario

secuelas y lo reconozco y afrontamos la situación con realismo y responsabilidad por lo tanto nada de autocomplacencias para quien le parezca que esa es la actitud y disposición del gobierno vasco he escuchado comparaciones sobre la evolución del empleo

la señora quiroga ha dicho que no querría entrar en comparaciones porque inmediatamente podríamos contraponer

en todo caso se dice que españa está reduciendo el desempleo más que euskadi y es cierto tanto que euskadi lo reduce más que alemania pero a pesar de ello

es mucho peor que en euskadi y la de euskadi es peor que la de alemania

lo importante es que la evolución del empleo en euskadi señora quiroga es consistente con la evolución del producto interior bruto eso es lo relevante

un dos coma siete por ciento y el empleo un uno coma siete por ciento y esto significa que parte del crecimiento

no es consuelo pero la realidad es que en enero haciendo referencia a lanbide también como se ha hecho había ciento setenta y dos mil personas inscritas en lanbide en enero

personas inscritas en lanbide y voy a dar otro dato en enero se ha hecho referencia también a la afiliación a la seguridad social en enero había ochocientos setenta y siete mil personas afiliadas a la seguridad social

y en agosto hay ochocientos ochenta y cinco mil crece el empleo crece la afiliación

yo creo que la senda es positiva que tenemos que seguir impulsando el programa de reactivación económica y empleo pactado con el partido socialista de euskadi el objetivo ciertamente es

no es de la calidad suficiente lo compartimos y lo he denunciado públicamente también en foros sectoriales lo he reconocido pero reconozcamos todos que la creación de empleo y su calidad es responsabilidad también de las empresas también es consecuencia de la reforma laboral

entenderán que para crear empleo de calidad hay que empezar por crear empleo y hoy euskadi crea empleo reconozco que el empleo sigue siendo por lo tanto la asignatura pendiente en nuestra economía y debería ser

intervenciones a todas y a todos nos gustaría que se diesen las condiciones para emprender el diálogo entre empresarios y trabajadores ya de manera el gobierno lo ha fomentado lo he dicho y yo personalmente he pretendido hacerlo y deseo que después de la estabilización de las organizaciones pueda reemprenderse

ayudar a buscar consensos sociales el empleo por lo tanto si es una prioridad y para ello estamos mejorando la capacidad de lanbide

y el futuro pasa por trabajar capacidades y no tanto curriculums estamos aumentando

a la intermediación laboral y a lanbide estamos aumentando el número de empresas que usan lanbide para completar sus plantillas el año dos mil trece teníamos tres mil novecientos noventa empresas ofertantes de empleo

las que están inscritas en lanbide el reto es atender las demandas de las empresas y para ello se realizan también programas específicos de formación de empleo y ejemplos tenemos petronor tubos reunidos mercedes gestamp entre otros que podríamos poner tenemos ocho programas destinados a fomentar el empleo juvenil invertimos veinte millónes en los planes locales y comarcales de empleo destinados principalmente a desempleados de larga duración se ha hecho alguna referencia también a los jóvenes

por el consejo de la juventud de españa bien el reto es que los jóvenes que salen fuera tengan la oportunidad de volver

los que salgan fuera que tengan la oportunidad de volver no es tanto retenerlos

tengan la oportunidad de volver necesitamos su conocimiento y necesitamos su experiencia y es cierto que jóvenes vascos buscan oportunidades fuera de euskadi es cierto

pero no se pueden hacer afirmaciones catastrofistas como se hicieron en la aportación de determinados datos sin mirar las razones que hay detrás de cada dato un ejemplo en estos tres años el propio gobierno vasco ha dado mil cuatrocientos cincuenta becas a jóvenes para que tengan una experiencia profesional en el exterior hemos apoyado mil ochocientos treinta y ocho proyectos para la internalización de empresas vascas el pasado curso tres mil jóvenes de nuestras universidades o de nuestros centros de formación profesional al exterior a seguir estudiando parte del futuro de nuestros jóvenes es saber estar formarse y trabajar en un nuevo mundo global lo estamos fomentando el reto que tenemos es insisto que esos jóvenes que han salido por uno u otro motivo puedan volver y reconozco que tenemos un ámbito de mejora poner a disposición de nuestras empresas ese conocimiento de quienes han salido a formarse y trabajar al exterior mostrar ese talento para devolverlo al país

por lo tanto euskadi tiene pese a la crítica tiene estrategia económica nuestra estrategia económica se sustenta en cuatro patas

la primero de industria primero de internalización primero de innovación y claro que tenemos política industrial y a los hechos me remito

convenios para dar capacidad a las sociedades de garantía recíproca

programas de mejora de las empresas vascas industria cuatro punto cero

consorcio de internalización con diputaciones y cámaras de comercio nuevo programa global lehian con más de mil empresas

asistencia a empresas vascas para licitaciones en el marco de organismos multilaterales plan interinstitucional de apoyo a la actividad emprendedora con las diputaciones forales

extensión de la banda ancha a los polígonos industriales esto es política económica para un gobierno inactivo creo que no está nada mal

euskadi decidió hacer política industrial en los años mil novecientos ochenta y salvamos nuestra economía y nuestra industria hoy

y vamos a garantizar el futuro de nuestra economía porque

en euskadi tenemos un veintitrés coma seis por ciento de economía industrial y buena parte de nuestro producto interior bruto

empresas tecnológicas el turismo y el comercio por otra parte representan el dieciocho por ciento del pib y tenemos casi con todo tenemos un ciento veintidós por ciento del pib de la unión europea un ciento veintidós por ciento

de la unión europea tenemos tasas de desempleo inferiores a nuestro entorno tenemos un empleo más estable y de calidad

pero la situación de partida es mejor que en otras zonas se ha apelado también como en ocasiones anteriores en debates que se han suscitado en esta cámara a la innovación

de la acción del gobierno y es una política de país y esta mañana lo he dicho he sido el primero en reconocer que tenemos que avanzar y lo he hecho en el seno del consejo vasco de ciencia

nos mantenemos en el entorno del dos por ciento en el contexto de una larga y profunda crisis que nos ha llevado a priorizar las políticas públicas sociales euskadi invierte un uno coma veinticuatro por ciento nuestro referente

y unido a lo que es la innovación como eje fundamental y también no solamente que se concrete en lo que es la aportación presupuestaria estamos

reconozco el esfuerzo de la iniciativa privada y así he mencionado también antes la colaboración público privada la iniciativa privada comprometida con el plan de

millónes de inversión privada hasta dos mil veinte un apunte al partido popular y a su referencia a bajar los impuestos mire la mejor receta fiscal

cincuenta reformas fiscales en tres años para subir impuestos y luego bajarlos a seis meses de las elecciones y esto es lo que ha hecho el partido popular

una reforma fiscal que entró en vigor el uno de enero de dos mil catorce y lo que

garantizar la certidumbre y creo sinceramente que sería

llevar a cabo una nueva modificación de nuestra fiscalidad cuando aún no se ha podido evaluar la reforma aplicada y tenemos también en el ámbito de la fiscalidad y también en este apartado un plan conjunto con las diputaciones forales para atajar el fraude fiscal usted quiere datos concretos y yo le digo también sabe usted de las respuestas del consejero de hacienda y finanzas

que se ha avanzado más que nunca en con acuerdo institucional con medidas claras con medidas transparentes

y que se han suscrito convenios para el intercambio recíproco de información beste atal bat gizarte politikak

hau erakunde guztien eginkizun bat da en relación a las políticas sociales

no ha reducido su esfuerzo en políticas sociales lo ha incrementado y voy a dar datos en el año dos mil euskadi destinaba setenta millónes

en dos mil diez eran trescientos ochenta y cinco millónes en el año dos mil diez hace cinco años y este año serán casi quinientos millónes

diecisiete millónes a la conciliación y este año serán

hemos puesto las bases para el desarrollo de una cartera de servicios sociales equilibrada se va a desarrollar la ley de vivienda y las políticas de garantía de ingresos conciliación y familia también se han mantenido en sus principales prestaciones no llegando

estamos mejorando también la gestión de la renta de garantía de ingresos y creo que es importante subrayar que el tiempo de tramitación es de cuarenta y seis días cuando hace dos años era de ciento dos días seguimos luchando contra el fraude se suspende una media

por incumplimiento de sus deberes se investigan todas y cada una de las denuncias que se reciben en los servicios de lanbide

no vamos a tolerar ni el más mínimo abuso del sistema ni por supuesto del fraude

y hoy estamos defendiendo ante la comisión bilateral de cooperación con el estado la ley de vivienda aprobada en este parlamento siguiendo con los servicios esenciales y también por referencia que se ha hecho a osakidetza yo quiero destacar el nivel de calidad del servicio vasco de salud es un referente en las políticas públicas de europa

y no se trata solamente de fotografías señora mendia la ope actual es de mil catorce puestos de trabajo

pero tiene que ver con lo que usted ha denunciado la tasa de reposición aprobada por el gobierno español y esa a la que yo reivindicaba el cincuenta por ciento el hospital universitario de álava está en marcha se han iniciado las obras del hospital de santiago

nunca hemos apoyado el copago farmacéutico y somos curiosamente la única comunidad que hemos puesto en marcha medidas de compensación y aquí hay partidos que tienen responsabilidad en gobiernos de comunidades autónomas en el estado español

pese a lo que se ha dicho también firmando un concierto y dando estabilidad económica y terminaremos con el despliegue de las organizaciones sanitarias integrales osakidetza ha tratado por otro lado también se ha hecho mención al tratamiento de la hepatitis cien

a más de setecientos personas con los nuevos antivirales de hepatitis cien con un coste superior

y se espera que para final de año haya tratado a más de mil personas

desde julio se puede consultar en internet la situación en lista de espera para procedimientos más frecuentes y relevantes la educación también ha habido una apelación a la educación

en la estabilidad y el consenso comparto que tenemos que materializarlo en una ley de educación vasca así lo he dicho también esta mañana y así está previsto en nuestro plan de gobierno

que es preservar el espíritu de consenso para esa futura ley de educación vasca y es un objetivo del programa de gobierno y del propio heziberri dos mil veinte

se ha hecho también una referencia en el apartado de educación a la investigación tengo que insistir

lo relevante es el acuerdo alcanzado en el propio plan de ciencia tecnología e innovación y también destacaría el plan universitario como respuesta

como digo falta de acción falta de concreción creo que con las respuestas que he dado queda suficientemente rebatida esa acusación pero en todo caso esta mañana en mi discurso he anunciado setenta medidas para los próximos meses tenemos estrategia tenemos programa

y tengo que decir que el gobierno está cumpliendo y que todo lo comprometido en el plan de gobierno se está cumpliendo y también hemos cumplido pese a lo que se diga el programa

y segundo dijimos que el gobierno aprobaríamos veinte proyectos de ley en el año dos mil quince y los aprobaremos otra cosa bien diferente es

en el parlamento porque ha habido grupos parlamentarios también o portavoces que estos días pasados han reconocido públicamente

en relación a activar o a ralentizar lo que pueda ser el debate de los proyectos de ley aprobados por el consejo de gobierno y traídos a esta cámara

el objetivo central por lo tanto del plan de paz y convivencia y así lo reflejamos desde el primer momento es el encuentro social nadie debe arrogarse el protagonismo de la paz y este gobierno desde luego no está trabajando en el ámbito de la paz

o de arrogarnos nada que corresponde al conjunto de la sociedad ni partido ni mucho menos eta debería arrogarse el protagonismo de la paz

una y mil veces dejemos a un lado la exageración

y lo que es mucho creo que también es la declaración de las víctimas del programa

el eje central no debemos situarlo en lo que pueda ser insisto el capital para los partidos políticos sino en el encuentro social

yo digo que defendemos la memoria para todas víctimas me reuní con las víctimas el pasado cuatro y cinco de junio como anteriormente hace ya

insistir en la idea de que el gobierno vasco o el plan de paz y convivencia establecen categorías de trato

en reconocer la violencia de eta la injusticia de la violencia de eta de los abusos policiales del batallón vasco español o del gal el problema es que no todo estamos de acuerdo en reconocer la injusticia de los asesinatos cometidos por eta y esta es un apelación directa a la izquierda abertzale y creo que sobre esta cuestión me he manifestado rotundamente cuantas veces he tenido ocasión

la izquierda abertzale elude un pronunciamiento claro que zanje el pasado

que nunca debería de haberlo hecho y esta es una asignatura pendiente la violencia fue un error y una injusticia y no reconocer el error perpetua sus consecuencias en relación a los retratos de las víctimas voy a dejar clara una idea

homenajear la militancia en la violencia o terrorismo es incompatible con la política de víctimas comprometida con los derechos humanos que defiende el gobierno vasco y todo acuerdo

ha de llevar implícito el reconocimiento de la injusticia de cualquier forma de violencia o de terrorismo nosotros no vamos a estar parados porque estar parados

la sociedad quiere que instituciones y partidos trabajemos juntos y en este punto de trabajar juntos reitero señora quiroga en vez de anunciar

habría que ver el resultado de lo que pudiera ser un debate sobre esa cuestión antes de que se cree la ponencia planteada yo le plantearía que se implique y trabajen en las que ya existen en este parlamento

para esas cuestiones que ustedes en la pretensión de una ponencia de libertades y convivencia querrían plantear no cree usted que están ya suficientemente manifestadas las posturas

la pasada legislatura de todas formas si quiere otra ponencia insisto no se la ofrezca al lehendakari es una cuestión a traer aquí al parlamento y a ofrecerla por lo tanto al respeto de grupos parlamentarios

me he interesado también la referencia a la arquitectura institucional interna

que el debate de la reforma de la ley de territorios históricos y el debate del nuevo estatus político de euskadi

que se están tratando además en dos ponencias diferentes de este parlamento que las dos cuestiones son relevantes y a las dos les he dado la bienvenida

pero que son distintas que las instituciones trabajen en una misma materia no quiere decir que se pueda ahorrar el gasto que usted anunció públicamente

que demandamos como prioridad las políticas de empleo señora mendia y promoción económica algo le sonará a usted por la responsabilidad también que al partido socialista de euskadi

el dieciocho por ciento de esa cifra que usted dijo públicamente está usted proponiendo realmente que eliminemos estos recursos ejemplo la inversión en el metro de bilbao la comparte el gobierno vasco con la diputación cree usted que sería mejor que la diputación dejara de aportar su parte

se ha planteado también en relación a la gestión de la seguridad social y las pensiones que pueden llevar a euskadi a la quiebra o a la ruina y eso significa que a mi modo de ver y tal y como también lo ha dicho el señor egibar

españa ya está en quiebra o en ruina pero el sistema de pensiones de españa tiene problemas de viabilidad futura por eso el pacto de toledo por eso señora quiroga

de modificación del gobierno español y del partido popular y las ideas de sacar prestaciones del sistema euskadi no tiene más problemas de viabilidad que los que tiene españa tiene menos y le digo un dato señora quiroga en euskadi cotizan

en españa solo cotizan cincuenta y seis y un sistema es más viable cuantas más personas coticen creo que la diferencia está clara

que se cumpla el estatuto que se cumpla el estatuto la gestión económica o la gestión del régimen económico de la seguridad social artículo dieciocho punto dos

y que euskadi gestione las pensiones y lo haremos con rigor y las garantizaremos

va a ser una ruina cuando la ruina está en españa o es que dudamos de la capacidad que tengamos los vascos y vascas y no me refiero al partido nacionalista vasco o al gobierno vasco para implementar las medidas que sean necesarias para garantizar la viabilidad del sistema

pero es que además estamos hablando de la gestión del régimen económico de la seguridad social artículo

gestión gestionamos la sanidad y está garantizada gestionamos la educación y está garantizada gestionamos la protección social y está garantizada

las pensiones estarán garantizadas que el pp el partido popular

somos una sociedad autorresponsable repito no nieguen ustedes la transferencia por una crítica

mal y que esto va a ser una ruina no va a ser al contrario pero no sea paternalista en ese sentido

mal cumpla el estatuto repito además euskadi tiene una tasa de ocupación del sesenta y cuatro por ciento y españa del cincuenta y seis por ciento y lo que es más importante creo que en la confianza de la ciudadanía los pensionistas vascos no tienen ninguna duda

del gobierno vasco cobrarán porque siempre hemos cumplido están

por lo tanto la posición política del gobierno vasco sobre el nuevo estatus político para euskadi la ha reflejado ya esta mañana y la reflejo también en este debate y he trasmitido el deseo de un pacto político para la convivencia

no renunciamos a los derechos del pueblo vasco y estamos preocupados por el incumplimiento y degradación sí insisto degradación del estatuto

el estatuto no obstante tiene un gran valor y queremos recuperar el espíritu de pacto queremos garantías

y queremos adaptarlo a las necesidades del país y a la realidad de europa nadie puede negar que ha habido una degradación del espíritu del pacto estatutario y nadie puede negar que ha habido una degradación del autogobierno

ya contempladas y gestionadas por las instituciones vascas no digamos ya en las que están pendientes

mediante leyes de bases nadie puede negar que hay en ese sentido una jurisprudencia también en base

del tribunal constitucional el debate de la reforma de la constitución española no garantiza que se vaya a atender los deseos de la sociedad vasca y esto lo tengo presente

para euskadi sería interesante una modificación de la constitución española si permite desarrollar la disposición adicional primera de reconocimiento de los derechos históricos

presentar la ley de empoderamiento como iniciativa de la ciudadanía de

insisto que sería interesante una modificación siempre y cuando permita el desarrollo de la disposición adicional primera de reconocimiento de los derechos históricos

y avanzar en la construcción política de euskadi señor maneiro

catalanas y a los resultados de las elecciones generales cuando estoy invocando el pacto

estoy invocando el incumplimiento del espíritu del pacto estatutario

ley orgánica estoy invocando la disposición adicional primera de la constitución española los derechos históricos reconocidos y amparados

por lo tanto avanzar en el nuevo estatus político no requiere estrictamente una reforma de la constitución española

sí requiere una voluntad y una visión política decidida

soy claro lo he dicho esta mañana soy nacionalista vasco militante del partido nacionalista vasco

y de la misma manera que la disposición adicional del estatuto de autonomía

y por ser lehendakari soy consciente de lo que es mi responsabilidad institucional no hace falta que usted me recuerde que soy representante ordinario del estado

si es lo que estoy haciendo reclamar el cumplimiento de la legalidad ahora bien también le devuelvo la pelota señor maneiro

yo no renuncio a los principios que tenga el partido nacionalista vasco

y en esta condición le hablo como lehendakari y se lo he planteado también esta mañana y lo planteo al conjunto de formaciones políticas con representación parlamentaria

el pueblo vasco no ha aceptado no acepta y no puede aceptar que su voluntad mayoritaria y en la actualidad democráticamente expresada pueda ser alterada suplantada o diluida por o en otras voluntades

y le recuerdo nuevamente y recuerdo a todo portavoz toda portavoz

el régimen autonómico no supone la renuncia del pueblo vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia y esto señor maneiro esto señora quiroga desde una concepción de historicismo pero también de decisionismo de ambas conjuntas

no provienen de la constitución española sino que se adaptan a ella invito nuevamente a que leamos el artículo primero

de la constitución española sino que se adaptan a ella al determinar que es el pueblo vasco es el pueblo vasco y nadie más que el pueblo vasco

y también esto es nación foral y podíamos hablar también en este sentido

y podríamos debatir también sobre lo que es el derecho de autodeterminación y el derecho de autodeterminación no para la secesión sino el derecho a la autodeterminación también

y es esto lo que reivindica el partido nacionalista vasco con el artículo primero

que los poderes de la comunidad autónoma vasca no provienen de la constitución española que es lo que dice el artículo uno del estatuto de autonomía de gernika señor maneiro con sus gestos una vez más

el negacionismo absoluto pero el problema es

la negación de lo que fue la voluntad mayoritariamente expresada por la sociedad vasca en el año mil novecientos setenta y nueve esto es lo grave

no lo hicimos ni con la constitución española que incluye la disposición adicional

de nación foral bien nación foral yo creo sinceramente que es una nación construida sobre la base de nuestros derechos históricos insisto en la combinación de historicismo y decisionismo

que han representado y representan la constitución del pueblo vasco a lo largo de la historia

lo que nos hace singulares y podríamos hablar de cataluña

en el periodo de la transición democrática y podríamos hablar de lo que fue el compromiso de los gobiernos

de no retornar al estado español hasta en tanto no hubiera una democracia consolidada y podríamos recordar cuál fue la actitud del gobierno en el exilio del gobierno catalán en el exilio frente a la del gobierno vasco y lo respetamos

y respetamos la decisión que adoptaron los partidos políticos catalanes a lo que fueron sus derechos históricos o pudieran haber sido y lo respetamos como respetamos el camino que ahora han adoptado pero nosotros somos singulares y somos singulares

nación foral por lo tanto respeto a la diversidad pluralidad desde un sistema institucional

participativo basado en la democracia consorcional a la vanguardia de las democracias más avanzadas un modelo que he dicho esta mañana y que no me canso de reiterar mira a europa a europa en defensa y desarrollo de nuestra singularidad basada en el principio de subsidiariedad también contemplando en el tratado de lisboa

en una estructura de estados compuestos y en un proceso de construcción europea complejo ezker abertzaleak berandu iristeko ohitura dauka

en todo caso plantea una ley de consulta no es una propuesta a la sociedad vasca por mucho que así lo diga señor arraiz

es un movimiento táctico no sé si para consumo interno como le he dicho antes o no sé si es un movimiento táctico que mira con el objetivo único y exclusivo del partido nacionalista vasco

antes se lo he dicho que no haga atajos y que en la ponencia de autogobierno

lleguemos a acuerdos mencionan ustedes permanentemente a cataluña como ejemplo y referencia como el modelo que tenemos que copiar yo insisto que cataluña emprendió su propio camino y modelo político

lo respetamos y hoy también los catalanes apostaron por un modelo de autogobierno y euskadi por otro basado en los derechos de los territorios forales los dos hemos sufrido la recentralización pero las

por las decisiones que se tomaron antes por las decisiones que se tomaron en el año mil novecientos setenta y ocho y mil novecientos setenta y nueve lo importante en todo caso para mí es que la sociedad catalana se pronuncie este domingo en libertad

será necesario estoy seguro el diálogo y la negociación y será necesario por lo tanto arbitrar una respuesta política a una cuestión política bilateralidad las decisiones unilaterales del estado el incumplimiento del estatuto la recentralización

de la degradación del espíritu del pacto y de la degradación del estatuto y la degradación también en base a lo que es la legislación invasiva y lo qué es la jurisprudencia y son necesarias garantías de cumplimiento esto es la bilateralidad que una parte del pacto no pueda imponerse y alterar el pacto

y lo reitero nos ha dado bienestar cohesión y la mayor institucionalización de la historia del pueblo vasco el estatuto ha sido el instrumento jurídico político que ha permitido articular la convivencia entre los vascos y entre los vascos y el estado y si algo

la confianza en nuestras instituciones ha permitido alcanzar un nivel de bienestar y justicia social como no habíamos conocido con anterioridad y considero sinceramente que la arquitectura jurídica e institucional con que cuenta euskadi

para emprender el proceso de una nueva articulación política y jurídica y reitero también que tenemos una gran oportunidad como le he dicho esta mañana en avanzar en la colaboración

de navarra colaboración con navarra y enmarcarla en la colaboración transfronteriza bien no se cumple el estatuto hay veinticuatro materias pendientes de transferir a euskadi y otras ocho en diferentes grados de ejecución se quiere

y por conflictos competenciales además de lo que hemos dicho en cuanto a materias y funciones pendientes de ser transferidas podría decir también que

once recursos de inconstitucionalidad cinco conflictos positivos de competencias ante el tribunal constitucional y tres conflictos ante el contencioso administrativo el estado evita mantener una relación bilateral y pactada carecemos

necesitamos que el nuevo estatus político de euskadi sea respetado y contemple garantías de cumplimiento el reconocimiento y la bilateralidad suponen el blindaje del pacto estatutario y dotar de ámbitos paritarios para diseñar las políticas y dirimir los conflictos y reitero

necesitamos las competencias necesarias para garantizar el diseño de país que queremos es una necesidad evitar que se sigan produciendo actitudes

democrática desde el primer día de gobierno nos hemos marcado como prioridad atender la crisis garantizar los servicios y la cohesión reactivar la economía

esfuerzo por lo tanto la prioridad del gobierno es la salida de la crisis porque es una necesidad urgente pero señoras y señores

para el futuro de euskadi quiero concluir mi participación en este debate de política general remarcando la voluntad del gobierno vasco por hacer avanzar euskadi

desde la colaboración desde la cooperación necesitamos un proyecto compartido de país y estamos trabajando para aunar las voluntades que lo hagan posible euskadi necesita de una acción coordinada y conjunta de las administraciones vascas euskadi necesita del diálogo y del acuerdo político necesita de estabilidad y de confianza en los momentos que vivimos importantes

euskadi necesita de la implicación privada de la colaboración público privada y de un consenso social que permita mantener la buena dirección euskadi es un proyecto común incluyente social y solidario euskadi nos necesita para construir el futuro económico y social

y para construir un nuevo proyecto político compartido y pactado y en este punto el gobierno va a mantener el trabajo emprendido hace tres años en tres compromisos compromiso con el empleo la reactivación económica y las políticas sociales

conscientes de la necesidad de seguir gestionando desde el rigor y la estabilidad económica asentar la reactivación económica y crear más empleo y que sea de mayor calidad y diseñar un proyecto de futuro que durante los próximos meses tendrá el centro de actuación en el empleo la innovación y la estrategia de euskadi basque country como visión abierta y global del país

y el compromiso con un nuevo estatus político y este parlamento por su parte creo que debe culminar los trabajos de la ponencia del autogobierno reitero mi respeto

parlamentario y emplazo a la búsqueda de un diagnóstico común que nos permita un nuevo pacto de futuro político para euskadi un nuevo estatus político y quiero terminar

también se ha hecho una apelación a ello con un mensaje de ilusión euskadi tiene futuro la sociedad vasca es fuerte es trabajadora y en cada momento de su historia ha sabido tomar el rumbo adecuado

me he referido en la intervención de la mañana a quienes nos precedieron y los que nos precedieron en cada momento supieron tomar las decisiones que hoy han hecho que este país sea moderno cohesionado y competitivo

la audacia y la inteligencia necesaria para garantizar un nuevo futuro económico social y político se lo debemos sí a quienes nos precedieron pero sobre todo se lo debemos a quienes nos sucederán a esa generación de jóvenes

y que su futuro está en euskadi porque euskadi tiene futuro nire esker ona eusko abertzaleak legebiltzar taldeari adieraziz bukatzeko

muchas gracias presidenta gracias señor lehendakari la verdad es que yo al inicio de su intervención le escuchaba el repaso que hacía de mi propia intervención y pensaba pues sí

y ciertamente he estado bastante contundente y creo que he hecho una buena intervención porque creo yo que la oposición parlamentaria no está para decir las cosas que haya podido hacer bien

señalar donde están los problemas y es eso lo que yo he hecho no he sido por lo tanto catastrofista ni mucho menos sino lo que he planteado con datos

tienen muchos ciudadanos vascos porque ciertamente me ha llamado la atención en su primera intervención que usted no ha hecho referencia a nada de lo que yo le he planteado en mi primera intervención

a la temporalidad del empleo en relación al incremento o mantenimiento de la pobreza en relación al incremento de la desigualdad que se ha producido durante estos años en euskadi

no le gusta pero la crítica es muy importante usted está aprendiendo mucho en este parlamento desde que es lehendakari a que sí a que está aprendiendo mucho está aprendiendo mucho no gracias al señor egibar está aprendiendo mucho gracias

que le señalan cuáles son los errores que este gobierno o que usted mismo

cometiendo por lo tanto nuestra obligación es señalarle cuáles son sus errores que es aquello que no ha hecho

agradecerme a mí y agradecer al resto de grupos

cuando usted deje de ser lehendakari mirará hacia atrás y dirá pues sí efectivamente aprendí mucho mientras fui

de la misma forma por cierto que yo mismo estoy aprendiendo mucho en este parlamento desde el año dos mil nueve

la sociedad vasca usted me dice que efectivamente al comienzo de la legislatura teníamos ciento sesenta y nueve mil desempleados y a día de hoy tenemos ciento cincuenta y cinco mil cierto enhorabuena

sobre todo a esos ciudadanos que han podido encontrar un trabajo pero sigue habiendo muchos problemas tenemos empleo parcial temporal y precario

el empleo que se está creando durante los últimos meses es un empleo parcial temporal y precario y que sigue habiendo multitud de problemas y que hay pobreza energética y que hay pobreza infantil y que miles de jóvenes en los últimos tiempos se han ido de euskadi cómo no voy a recordárselo

uno de los miembros más contundentes de la oposición a su gobierno se lo tengo que recordar usted dice estamos mejor que hace un año algunos ciudadanos vascos están incluso peor hay muchos ciudadanos vascos que están incluso peor que hace un año

y al menos le he obligado a que en su segunda intervención hable algo más de manera más insistente y más clara en relación a esos problemas usted dice que en fin estamos mucho mejor que

y pocas veces mira hacia el norte por ejemplo euskadi tiene una de las tasas de paro más altas de europa

usted y su gobierno no han sido capaces de resolver esos problemas y ahora nos presentan setenta medidas para corregir la situación

de momento usted y ustedes no han conseguido resolver esos problemas gravísimos que tiene la sociedad muchos ciudadanos vascos al menos dice que euskadi es líder en todo estupendo que sea líder en todo

antes de que usted llegara a la presidencia del gobierno vasco ya era líder no ha cambiado nada en relación a eso y tampoco tiene mucho mérito estar mejor que el resto de españa

de actividad económica etcétera etcétera por lo tanto no se compare tanto con el resto de españa como habitualmente hace y mire cuál ha sido la evolución de la economía

de los ciudadanos vascos y de esos ciudadanos que lo están pasando ciertamente mal por cierto la diferencia respecto al resto de españa es menor se está acortando e incluso hay quien habla de una españolización de la economía vasca como consecuencia de que la industria crece menos que los servicios y eso también es un grave

se mantenga pero lo que haya que hacer para corregir

pues hagámoslo que es lo que yo le he planteado cuál es su propuesta concreta en qué hemos quedado la nación foral

renuncia usted a la independencia a que no renuncia usted a la independencia no renuncia usted a la independencia por eso tengo que yo

qué es lo que dice la constitución española qué es lo que dice la legalidad vigente o cuáles son los límites porque sé que usted quiere alcanzar la independencia y yo haré todo lo posible para que usted no consiga ese objetivo le digo porque

fuera de la constitución española el derecho a decidir la bilateralidad política la nación foral

perjudiciales para la convivencia ciudadana y para el bienestar

la seguridad social o las pensiones eso sería perjudicial sería muy perjudicial nos iría mucho peor lo que pasa que usted plantea como avance cualquier propuesta nacionalista

que cualquier nacionalismo usted dice no cuanto más autogobierno mejor pues yo creo que en muchas ocasiones no lo que pasa que usted plantea eso como

parecer no es ningún avance para mí no hay nada más reaccionario que romper la ciudadanía común que mantenemos con el resto de ciudadanos españoles no hay nada más reaccionario que eso

compartida que tenemos con el resto de ciudadanos españoles y por lo tanto tengo que decirle y lo reitero que efectivamente usted se mantiene agazapado agazapado a la espera de lo que ocurre en cataluña y a la espera de lo que ocurre en las elecciones generales ciertamente así lo creo porque yo

y estoy convencido de que harán todo lo posible para alcanzar la independencia y por lo tanto levantar nuevas fronteras entre conciudadanos y a eso me voy a oponer absolutamente siempre hablaba usted de degradar

para mí desmembrar el estado es degradar romper la ciudadanía compartida es degradar la convivencia y por lo tanto mi obligación es ponerlo encima de la mesa y recordárselo usted habla de nación foral y de derechos históricos de manera permanente en mi opinión son conceptos

y profundamente reaccionarios yo creo en la ciudadanía democrática que es el conjunto de derechos deberes y garantías reconocidos por el estado a cada uno de nosotros no están basados en ninguna identidad cultural étnica

o racial predeterminada sino en nuestra pertenencia como miembros a la institución constitucionalmente vigente que establece las reglas de juego que compartimos

cada cual puede tratar de diseñar el perfil que quiera dar a su vida sea para asemejarse a unos

de todos tal como dijo fernando sabater yo defiendo esto la ciudadanía democrática más que viejos conceptos y rancios conceptos como nación foral o derechos históricos tres años perdidos efectivamente usted quiere reformar el estatuto por qué no mira

un informe realizado por el gobierno vasco anterior en relación a esos cuatrocientos millónes de euros que nos ahorraríamos si se llevara a cabo una profunda reforma de la ley de territorios históricos y si elimináramos las duplicidades y las ineficiencias

no le interesa no quiere reformar el entramado institucional vasco no quiere reformar la ley de territorios históricos y no quiere reducir ni modernizar el entramado societario si esto se hiciera mejor nos iría a todos

para ponerlos a disposición de la sanidad de la educación del empleo de las becas de las ayudas a la conciliación de las ayudas a la maternidad

y más para vivienda si se hiciera eso ahora dice que sí que va en fina a debatir ese proyecto

de territorios históricos pero lo cierto es que durante tres años ha rehuido permanentemente el debate en fin voy terminando

paz y convivencia critica usted que yo le critique no me queda otro remedio porque si atendemos a los hechos ocurridos ya digo especialmente en las últimas semanas cómo no voy a ser crítico si ustedes critican las detenciones de miembros de eta o si al menos no las celebran o si al menos miembros de su partido político

a etarras que fallecieron por causas naturales cómo no vamos a ser críticos

para homenajear a determinadas víctimas en determinados municipios y resulta que invitan a eh bildu que no condena a eta y no invitan al partido popular con la excusa que el partido popular no tiene alcaldías en esos municipios eso es una cosa

lamentable y por eso digo que ustedes fomentan con ese tipo de propuestas

y la equidistancia que les caracteriza en fin únicamente quiero terminar diciendo que yo también creo en euskadi usted decía en su primera intervención en un momento determinado que usted cree

el problema es que yo no creo en su gobierno no creo en el partido nacionalista vasco y por lo tanto seguiré haciendo oposición a su gobierno al partido nacionalista vasco

gracias señora presidenta lehendakari no sé si es que usted ya lo tenía escrito y no me ha escuchado esta mañana esta tarde perdón

en ningún momento en toda mi intervención y creo estar segura de eso

pero es que estoy tan segura de que no he dicho que estemos en una situación peor sabe por qué porque todo mi planteamiento

en valor dos datos que estaban en positivo y poner en valor esos dos datos me viene también bien a mí porque usted sabe que parte de eso también es por una serie de políticas que en el ámbito nacional se han tomado y que han dado buen resultado

que yo reconozco que la situación es mejor que en el dos mil doce lo que le he dicho y he tratado de argumentar con números a lo largo de toda mi intervención es precisamente que los vascos

y salir de la crisis a otro ritmo precisamente por la capacidad que tenemos y por el autogobierno que tenemos y por los instrumentos de que disponemos

el que no está a la altura de las circunstancias es este gobierno que no va al ritmo que no toma las decisiones con la rapidez y con la eficacia que debería tomar cuando le estaba hablando de la ejecución presupuestaria y que usted desde luego no me ha dado ninguna razón por qué esas ejecuciones

tan lentas sabe por qué es porque cuando este gobierno toma la decisión de poner en marcha una línea de ayudas para cuando

se pone en marcha para cuando esas solicitudes llegan al gobierno y finalmente esas ayudas llegan a los destinatarios

por eso no se ejecuta por la lentitud de este gobierno a la hora de poner en marcha esas actuaciones

que este gobierno no es dinámico porque no hace modificaciones porque no moderniza la administración para que sea más ágil y para que dé respuesta mucho más rápido a todas esas necesidades eso es lo que yo le he dicho esta mañana y por eso

nuestro autogobierno y nuestra capacidad desde su gobierno para ser más eficaces y acompañar a las necesidades de los momentos que estamos viviendo que son

rápidas y mucho más agiles aquí también usted nos ha hablado de la fiscalidad que no toca una bajada de impuestos yo creo que sí lehendakari yo creo que usted sabe que eso dinamiza

es que les hace salir a ustedes de su situación de confort en la que más o menos más o menos ya controla cómo va a ir la recaudación y eso les impide tomar decisiones y mantenerse

en la que no les incomoda la situación pero aquí no se trata de que este gobierno esté más cómodo sino que los ciudadanos dispongan de más recursos

son las primeras que están demandando esa bajada de impuestos que es lo que debería usted liderar

hemos hablado del fraude usted sigue sin decirme cuánto se ha recaudado del fraude

de esos planes que iban a poner en marcha sí lo ponía que iba a aflorar fraude fiscal

porque creo que este parlamento tiene derecho a saber cómo están avanzando esos planes en función de esos recursos de los que se iba a disponer y usted no ha dicho nada no ha entrado

los números con los que yo de una manera humilde pero creo que es

porque me parece que ese es el debate que nos merecemos los vascos cómo se está gestionando si se está siendo eficaz o no en el gasto y si ese gasto está teniendo realmente efectos y vemos que van mucho más lentos de lo que debería ser

me ha hablado de lanbide y es verdad yo creo que es muy

que el gobierno anterior vale tres años en septiembre tres años en septiembre

porque eran los campeones de la gestión tres años es que esa es la realidad por eso yo lo que les quería decir esta tarde es que esperábamos más

mucho mejores y que euskadi iba a vivir un reinicio y estamos viendo que no que no es así y los datos avalan que claro que vamos mejor porque la tendencia la inercia es de un cambio de ciclo pero que nosotros antes liderábamos y ahora no y usted se ha esforzado por explicarnos a todos que esta es la posición que nos toca jugar ahora que euskadi tiene que estar así y usted sabe que no

y que el problema es que este gobierno no está a la altura de la sociedad vasca

me ha hablado también que la falta de proyectos de ley o de leyes aprobadas es en parte por culpa del parlamento no por culpa del parlamento hombre

hombre no se escuden en eso claro si ustedes esperan al último año

de verdad los que tienen un impacto en la sociedad

si es evidente si es que los números cantan lehendakari ahora la culpa la tendrá el sistema el sistema

pasar por no sé cuantos informes hasta que se convierte en un proyecto de ley para eso están ustedes para reformar todo eso para agilizar también los procesos dentro del gobierno para la elaboración de los proyectos de ley si esto es viejo si es que llevo unos años aquí ya si todos los gobiernos se sientan ahí

esto siempre lo han dicho pero nadie llega ahí y realmente hace una reforma para ser mucho más ágiles

como lo son en otros parlamentos no son mejores que nosotros y van a un ritmo legislativo

que este más ejecución presupuestaria el señor egibar dice que por supuesto está convencido

estos son números estos son números y los números en este momento lo que nos dice

y se está haciendo un cálculo se está haciendo un cálculo

la economía vasca quisiera también referirme brevemente al tema de las pensiones porque lehendakari

dar lecciones de paternalismo al partido nacionalista vasco

de una realidad me reconoce que hay

sí bien yo los últimos cálculos que conozco es que se pensaba equilibrar eso

eso se lo va a contar a los vascos claro vamos hacer los números y a parte está siempre tentación que tienen

también hay una disposición que dice que no se romperá la caja única ah no tampoco no existe esa disposición ah bien vale bien bien tampoco nada vale el caso es lehendakari por ir a datos porque creo que hay que ser riguroso en esto la realidad en estos momentos es

un dos coma uno por ciento de tasa de reposición dos coma uno y nosotros en euskadi estamos en el cero coma ocho

esas pensiones cuando sabe que eso no es así y voy terminando

con dos cuestiones mejor tres si me va a permitir también un poco la presidenta

felicitado a varios parlamentarios yo también quiero felicitarle señor arraiz le deseo todo lo mejor

por el camino usted ha dicho que les va a contar una historia una historia en la que había dos bandos que se hacían mucho daño

tenga cuidado porque si le cuenta eso y le genera

en euskadi ha habido dos bandos que se han estado haciendo daño quizás dentro de unos años entiendan que están legitimadas o legitimados

y vuelve a empezar la historia mire yo tengo un hijo de catorce años

le he dicho que tenemos que respetarnos los unos a los otros independientemente de lo que pensemos que tenemos que ser respetuosos y que matar que matar siempre está mal nunca tiene justificación yo no le he explicado nada mas nada más porque no le quiero condicionar a mi hijo

porque no quiero que en él crezca la semilla del odio sobre esa base sobre esa base construiremos el futuro de euskadi

porque probablemente lo que le va a costar es contarles a sus hijos dónde estaba usted

y termino dos cosas nación foral lehendakari

basado en historicismo y decisionismo decisionismo lehendakari el decisionismo de schmitt le leo lo que dice el decisionismo

en la vida política esta doctrina tiene un rasgo específicamente autoritario que no se halla

si antes estaba preocupada esto merece una explicación mire yo voy a acabar presidenta

con lo que usted ha terminado esta mañana yo quiero agradecer a los vascos quiero agradecer de los vascos todos estos años su trabajo su dedicación su apuesta su riesgo su fortaleza para afrontar esta situación complicada

los partidos nacionalistas fundamentalmente han venido a marcar este pleno

forales porque es lo que más les preocupa a ellos pero los socialistas ya saben ustedes que lo que hemos hecho ha sido conjurarnos principalmente

y no porque lo digamos los socialistas sino porque lo dicen los propios vascos incluso los que votan a partidos nacionalistas les preocupa el empleo la educación la sanidad las políticas sociales esas son las cuestiones que les preocupan y en esos asuntos

mi intervención de esta mañana principalmente y trataré de centrarme ahora también porque cuando hablo de autogobierno estamos hablando sobre todo de competencias

en todas esas competencias que las tenemos que no tenemos que esperar a nadie para que nos las den porque ya las tenemos en el estatuto de autonomía

para llevarlas adelante con decisión pero también

ante todos ustedes el compromiso de los socialistas con el autogobierno para nosotros

como una mejor defensa de sus derechos y de sus libertades y nosotros queremos que el autogobierno sea útil a los vascos y lo queremos dentro de un proyecto compartido con españa y en europa esa es la propuesta de los socialistas nosotros no aceptamos ni propuestas de independencia ni derechos a decidir ni consultas cuestiones estas como la bilateralidad que es una renovación de otras cuestiones viejas o el nuevo hallazgo lingüístico de su gobierno para este pleno que es la nación

y tenemos mucho trabajo por delante y yo creo que no sería bueno perderse ni en palabras ni en nominalismos e ir a la raíz del problema tenemos la ponencia y nosotros creo que tenemos que centrarnos en lo que consideramos que es el problema principal del autogobierno

eso es la raíz del problema que podamos ejercer nuestras competencias para defender mejor a los vascos y desarrollar mejor sus derechos sociales

queda mucho trabajo por hacer en la ponencia eso sí lo comparto con usted señor lehendakari pero también es cierto que aunque usted

porque directamente a pasado usted y también el portavoz del grupo nacionalistas vascos a señalarnos el camino de cuál tiene que ser el resultado final de esa y le recuerdo los socialistas no compartimos las soluciones nacionalistas porque no somos nacionalistas pero sí compartimos con ustedes una cuestión que es revisar lo que tenemos hay que empezar también reconociendo que la autonomía vasca ha servido muy bien a este país que estamos mucho mejor como sociedad ahora y que si la reformamos en el futuro desde el consenso y la legalidad va a ser mucho mejor para los vascos yo le propongo que aproveche la ocasión del tiempo nuevo que se va a abrir en españa de una reforma constitucional para mejorar esa relación clarificar las competencias generar espacios donde se puedan dirimir las diferencias que existen entre los diferentes gobiernos y esa es nuestra propuesta y también como le decía en mi intervención aprovechar

la relación entre las administraciones vascas y por lo que le he oído en la replica sobre la ley de territorios históricos me ha dado la impresión de que no ha tenido demasiado tiempo para leer la propuesta pero sí he encontrado en usted un tono mucho más de encontrarnos que a diferencia del portavoz

que lo ha despachado con dos mandobles entonces me voy a quedar con esa predisposición suya al debate al acuerdo y a la búsqueda de consensos y nos daremos tiempo para ello también quiero volver a incidir en un tema que para nosotros es importante y que lo hemos dicho esta mañana no queremos perder esta legislatura en temas de convivencia y de memoria y la verdad es que

en esta legislatura se han ido deslavazando se han ido perdiendo el gobierno vasco en esta legislatura me sabe mal decirlo pero va a ser una legislatura perdida en memoria y en convivencia porque más allá de un puñado de titulares unas cuantas fotos y planes sin sustancia

y creemos también que esta es la gestión del partido nacionalista vasco en el gobierno vasco la gestión del partido popular sobre estos temas al frente del gobierno de españa tampoco la compartimos

como trae el señor maneiro estos temas a la cámara pero hay una cuestión que pese a esas diferencias que tenemos el pnv el partido socialista upyd y el partido popular hay algo en común entre todos nosotros entre usted señor urkullu

señor maneiro y yo misma y es que todos podemos decir sin ambages sin dar vueltas

el terrorismo que matar estuvo mal que nunca se debió de matar ni secuestrar ni torturar ni amenazar a nadie ni en nombre del estado ni en nombre de ninguna idea política

no es novedad no es noticia pero sería noticia señor arraiz que lo dijeran ustedes desde su bancada

porque usted ha hablado de sus hijos ha hablado del futuro de este país qué mejor servicio para el futuro de este país que ustedes hagan esa declaración

en la que los socialistas nos movemos en ese tema y no nos vamos a mover ni un paso atrás en esa cuestión de convivencia

nos vamos a centrar en los temas que interesan a los ciudadanos y que lo han dicho en reiteradas ocasiones que es su principal preocupación que es el empleo el empleo y la economía y los servicios públicos y mire yo le he reconocido y es verdad los datos son mejores hay menos personas apuntadas en lanbide yo nunca le voy a culpar a usted del desempleo porque usted no es culpable del desempleo ni de las causas de la cronicidad

exigirle que exprima al máximo las herramientas que el autogobierno ha entregado a sus manos el gobierno vasco tiene la mayor de las herramientas es el mejor ustedes no lo están explotando al máximo se están conformando con gestionar de una manera bastante pobre y nosotros y también lo sabe usted

ni una sola propuesta que pensemos que puede servir a los vascos que le puede servir a usted para reducir

para mejorar su situación porque para nosotros la

atender a los jóvenes atender a los desempleados atender a esas personas que están

sin esperanzas y estas son las cosas que le pedimos que haga no usted criticaba el plan que yo le he propuesto porque decía pues no hay ninguna novedad porque ya está incluido

en los últimos presupuestos partidas concretas sobre edificación sostenible formación a trabajadores en el desempleo en ese área en concreto porque

para así generar más potencia a la hora de ayudar a los desempleados nuestra sorpresa ha sido que no hemos encontrado

porque son temas que sabe usted que están en la mesa de diálogo social y que cuentan con el apoyo de empresarios sindicatos y en este parlamento cuenta con el apoyo de mi grupo por lo tanto aproveche ese respaldo no lo obvie usted porque el gobierno

recupero la mesa de diálogo social después de una década de no

y de no considerarla una herramienta útil y nosotros a usted le exigimos que en esta legislatura la convocara

unos acuerdos porque los sindicatos y los empresarios consideraban que era una herramienta útil que además en los países nórdicos en los que tanto nos gusta mirarnos para las políticas de empleo para las políticas sociales

las medidas que están ahí aprobadas saque adelante todas las políticas formación de los empleados que están en los ere de los trabajadores de en paro de larga duración en fin saque adelante todos esos planes

el presente y hay que gestionar las urgencias del presente sí efectivamente pero hay que hacerlo mirando al futuro sobre todo y consolidando ese futuro

ahora y en temas de protección social yo le vuelvo a incidir nosotros hicimos un pleno monográfico sobre pobreza y empleo ahí tiene usted un montón de resoluciones aprobadas por este parlamento

para construir bases sólidas para un crecimiento sostenible y social que acabe con esa brecha que se ha establecido entre los vascos fruto de la crisis

y algún otro grupo de la cámara también sobre el calendario legislativo yo no lo había mencionado no quería entrar al debate del calendario legislativo pero la verdad es que

y les deja en evidencia pero le voy a poner un ejemplo donde confluye todo en torno al gobierno y su grupo parlamentario el estatuto de la mujer agricultora

lo remitieron ustedes a la cámara en noviembre del dos mil catorce no se han pedido comparecencias por parte de los grupos el dieciocho de marzo ya tenían todas las enmiendas de todos los grupos la ponencia la preside el partido nacionalista vasco y no la han reunido hasta la semana pasada lehendakari eso no es culpa de los grupos parlamentarios le podría citar más pero en fin de verdad creo que quedan en evidencia y no está bien culpar a los grupos de la cámara de esas cuestiones

no nos tiene que agradecer el apoyo a su gobierno lehendakari no nos lo tiene que agradecer a los socialistas nosotros no apoyamos al gobierno vasco nosotros apoyamos a los ciudadanos porque queremos

sea mejor eso es lo que hacemos los socialistas y eso es lo que nos guía queda muchísima tarea para este último curso del mandato parlamentario le vuelvo a decir

están atendiendo pero de vez en cuando se despistan vamos a estar muy vigilantes para que no se despisten

los presupuestos tenemos los presupuestos vigentes y vendrán unos presupuestos a la cámara y tienen que servir para mejorar los del año anterior no queremos ningún recorte en esos presupuestos desde luego los socialistas no vamos a admitir ninguno ni en hipótesis como parece que es la que maneja su gobierno y si ustedes

facturas a otro año de un año a otro como ya detectó el tribunal de cuentas en el informe que presentó en junio en esta cámara será su problema será el problema de sus gestores económicos pero no quiero que sea el problema de los ciudadanos vascos entonces nosotros siempre lehendakari nos va a seguir encontrando y acordando con nosotros allí donde recortemos las desigualdades de los ciudadanos

ayudar al que sufre al que se queda por el camino por los efectos de la crisis pero también le quiero recordar como le he dicho en la intervención anterior que hoy nos estamos jugando el futuro

sea ambicioso tenga ambición de país y tome decisiones nosotros estaremos por no permitir ninguna distracción a su gobierno y apoyarle en aquellas cuestiones que vayan por ese camino pero no por

que vamos a contar y que hay que contar todo lo que ha sucedido en este país todo absolutamente todo lo que ha sucedido lo que nos han hecho lo que a mí me han hecho y lo que yo también he hecho

lo que vamos a contar también hemos dicho que

que la violencia es siempre un camino pernicioso y que aunque a veces se pueda pensar que es el único camino que es la única vía entonces también es un camino pernicioso esto no lo digo yo hoy aquí por primera vez esto no me lo he inventado yo no sé si lo ha dicho la izquierda abertzale sí lo dijo

de carrero blanco quien se le adjudica la categoría de víctima y argala el mismo argala

es nuestra historia es la historia de todos y de todas son las cosas que han sucedido en este país guk esan dugu gu garela bermea

tiene para repartir para todos parece que debería de ser

un poquito más humilde parece ser que su partido por su tradición política es la única que está limpia de toda mácula

ya tendrá luego usted otra vez oportunidad de volver a vomitar sobre la izquierda abertzale que es lo que mejor se le da en los últimos tiempos

creo que no es muy consecuente con esa actitud de autocrítica lo que ha sucedido con el tema de iñigo cabacas es decir el responsable policial

es nombrado jefe de la ertzaintza creo que eso no es lo que se puede entender

encima el secretario de paz y convivencia sea el que va a donde los familiares de iñigo cabacas a decirles que no va a ser posible esclarecer

creo que eso tampoco se corresponde con una lectura autocrítica que es la que piden para el resto

y por si tienen alguna duda se lo voy a decir claramente no les buscamos a ustedes

tampoco ustedes son tan importantes como para pensar que la idea de una

no buscamos al pnv en esa confrontación irremediablemente tenemos una confrontación este pueblo tiene una confrontación democrática con un estado que no lo reconoce ni lo va ha reconocer esté el pp o esté el psoe en el gobierno ni lo va a reconocer como su objeto de decisión esa es la confrontación democrática que existe

nos interesa la confrontación de este pueblo con ese estado que no les reconoce es la que queremos y es la que buscamos

eskatzen digutena los ciudadanos y las ciudadanas les importan más los temas de los que hablan ustedes pero luego no les votan tanto a ustedes

a los ciudadanos y las ciudadanas resulta que creo que los

precisamente de donde estamos planteando dejándoles decidir libre y democráticamente su futuro en lo político social y en lo económico eskerrik asko

cuando insistentemente reproduce un error un error no sé si de información o de otro tipo en todo caso usted

en lo que afecta a la parte de lucha contra el fraude y lo que son los resultados de la reforma fiscal

léaselo quinientos cincuenta millónes para los tres años y nutrientes son la reforma fiscal y la lucha contra el fraude míreselo o que se lo miren

mariano rajoy cuando de le dijo aquello de carácter unitario de la seguidas social el decía caja única no caja única no hay

y una cosa es la titularidad de los recursos y otra la gestión y la transitoria quinta

habla exactamente del convenio por lo tanto la transferencia está contemplada tercera cuestión

usted cifra el dos mil catorce o el dos mil trece

dónde están los superávit y le puedo hablar del dos mil al dos mil ocho y si quiere recalculamos los anteriores dónde han estado superávit ni le cuento si hacemos un comparativo de lo que son la financiación de la administraciones públicas que operan en euskadi quién qué superávit obtiene de todas todas obtiene el superávit el estado español luego si hacemos cuentas

la sociedad que no es de gananciales creo que las cuentas pueden salir en una dirección que usted no contempla bigarren gaia psoe autogobernuaren inguruan ez yo creo que no no tiene credibilidad

a reformar la constitución y ya verán ustedes pero hay una serie de hechos

uno aparte de lo que pueda ser la quimera o fantasía eso de la reforma constitucional

va a obtener esas mayorías de dos tercios o tres quintos pero bien dos actos ustedes han recuperado

el recurso previo de inconstitucionalidad a los estatutos de autonomía

lo han sacado del bloque de constitucionalidad cuando el estatuto de autonomía tenía una vía especifica si han sido ustedes

entre los informes que han solicitado hay uno que llama poderosamente la atención que es el que presenta el partido socialista su grupo donde se pide un informe a la cojua

para que determine los límites del debate porque algún

o participante entiende que se deslizan conceptos no se atreve a formular o el derecho a decidir o sujetos políticos que no deben ser objeto ni siquiera de debate

qué reforma va a salir de ahí yo creo que es una misión imposible la que están planteando ustedes desde luego a nosotros no nos van a convencer

en los últimos tiempos pero con respecto al estatuto de autonomía el lehendakari ha hablado

las posiciones de cada cual nosotros no estamos diciendo cosas que sean incoherentes o sea alguien se cree a estas alturas

aquel famoso consenso que le dio carácter político al estatuto de autonomía ese consenso desapareció hace muchísimos años

que fue el dos mil cuatro dos mil cinco la propuesta de reforma ni siquiera fue admitida a trámite en madrid se despachó

y estamos no sé si en la antesala de una posible reforma o propuesta yo creo que

si tenemos que hablar claro también es verdad que nosotros no vamos a participar en una operación de meterle purpurina al óxido no estamos en una operación de lifting

el momento histórico de que españa y euskadi se entiendan

tendrá que ser desde el reconocimiento mutuo

para establecer una nueva relación política y ustedes no lo ven

entonces les parece imposición lo suyo no ustedes dicen

pues también este parlamento ha aprobado una declaración hace muy pocos meses reconociendo el sujeto político pueblo vasco y su derecho a decidir

existir y de hecho existe la propuesta de pactar el ejercicio entonces yo no sé ustedes saben que somos nacionalistas vascos

no somos españoles no nos sentimos españoles entonces no tenemos nada ni contra españa ni contra los españoles evidentemente

como rezaba o recogía una pancarta en la diada en cataluña el pasado once decía aquello de no nos sentimos no queremos no necesitamos ser españoles qué parte de la oración no se entiende y sin embargo tenemos que convivir

articular un mecanismo de convivencia desde el respeto de las dos naciones o de los dos pueblos ahí está la diferencia

al que haya que reconocer sus derechos nosotros creemos que sí es más yo le

ustedes creen que la democracia española ha madurado ha madurado lo suficiente se ha modernizado lo suficiente

poder admitir un debate de esta naturaleza porque las posiciones del partido popular o del partido socialista no están homologadas en europa en europa los máximos dirigentes actúan de otra manera y el propio rajoy aludiendo al tema de cataluña ha internacionalizado

ha internacionalizado entonces si en europa se han articulado soluciones por qué en cataluña y en euskadi no es posible